buenos días a todos obviamente mantenemos lo dicho en todos los debates que se han producido en los últimos tiempos en relación a esta

desde el día cuatro de diciembre del año dos mil nueve que fue el día en que se debatió la toma en consideración de la proposición de ley popular para declarar festivo el día veinticinco de octubre como día del país vasco euskadiko eguna en primer lugar queremos decir muy claramente que nosotros lógicamente el juego de las mayorías y de las minorías parlamentarias y el cambio también de estas mayorías o minorías parlamentarias así en la pasada legislatura

veinticinco de octubre como día de euskadi porque había una mayoría parlamentaria para ello y a día de hoy hay otra mayoría que propone justo lo contrario

llevar a cabo la derogación de esta ley que se acaba de producir nos queda lamentar no solo el cambio de la mayoría parlamentaria producida

que no se hubiera aprovechado aquella mayoría de la pasada legislatura aquella mayoría supuestamente constitucionalista

para impulsar otro tipo de reformas que no se llevaron a cabo por dudas y miedos por falta de voluntad política y por falta de ambición política por cierto aquella decisión que se tomó durante la pasada legislatura no fue una imposición señor egibar es algo que habitualmente suele exponer y decir

de un debate parlamentario y fue consecuencia de una mayoría parlamentaria distinta a la actual por lo tanto fue una decisión perfectamente democrática y legítima hay quien ha venido a decir en los últimos tiempos que aquella decisión fue tan democrática y tan legítima

la decisión de ahora de derogar el día de euskadi yo diría que aquella decisión fue más democrática y más legítima puesto que

presente en este parlamento eh bildu que parece evidente que sigue sin cumplir la ley de partidos y por lo tanto no debería estar presente por eso digo que aquella mayoría

más democrática y fue más legítima que la actual tampoco podemos considerar esta ley que ahora se deroga como una ley más ya que tenía un alto contenido simbólico que es precisamente lo que el partido nacionalista vasco y eh bildu han pretendido derogar

planteamos las mismas razones ahora para oponernos a su derogación que las que defendimos en su momento para aprobar la ley que se pretende ahora derogar y que efectivamente se ha derogado lo importante para nosotros es que el estatuto de gernika es la normas básica

y junto a la constitución española lo que nos permite también vivir unidos al resto de los ciudadanos españoles y es precisamente ese consenso y ese lugar común lo que eh bildu y el partido nacionalista vasco han pretendido y pretenden podemos recordar que el estatuto fue aprobado con una participación de casi el sesenta por ciento del censo y que cosechó más del noventa por ciento de votos favorables algo que evidentemente es también muy importante nosotros por lo tanto reconocemos el marco jurídico que disfrutamos

como la constitución española aunque propongamos cambiarlo y efectivamente proponemos cambiarlo tanto uno como el otro a través de los procedimientos legales establecidos también proponemos reformar profundamente la constitución española y por eso no dejamos de ponerla en valor

ni de defenderla ni de celebrarla por lo tanto para nosotros lo importante es que es el marco jurídico que nos permite convivir juntos y junto con la constitución española unidos también al resto de los ciudadanos españoles es ciertamente llamativo que el nacionalismo haya querido festejar siempre

y que sin embargo proponga derogar un día festivo que pretende o pretendía celebrar aquello que nos une pero en fin el nacionalismo

sus propios intereses particulares acabar con todos los consensos que nos permiten vivir juntos y unidos al resto de los ciudadanos españoles ahora tienen mayoría

también podemos recordar cómo el gobierno vasco el propio señor consejero aburto decía hace escasos meses que se produciría división en el caso de promover su derogación esto es lo que decía el propio gobierno vasco

trasladaría a la sociedad un mensaje de conflicto daría la impresión de que no les resolvemos los problemas sino que se los creamos

y eh bildu producir división generar conflicto y crear problemas a los ciudadanos en todo caso nosotros nos parece importante y relevante celebrar haber podido celebrar el día de euskadi

lo importante es defender los derechos ciudadanos por la vía de los hechos en ese sentido para nosotros lo fundamental que debemos hacer los representantes políticos
es ocuparnos de los problemas reales de la gente maneiro jauna amaitzen jo mesedez y a día de hoy son muchos los problemas

hay que plantear medidas para salir de la crisis hay que plantear alternativas a los recortes sociales hay que defender medidas para regenerar la democracia hay que reducir el desempleo hay que luchar contra la corrupción hay que impulsar todas aquellas medidas que

importan realmente a los ciudadanos y nosotros es lo que vamos a seguir haciendo sea o no sea festivo

nosotros seguiremos celebrando el día de euskadi todos los días del año
a través de la defensa de los derechos de los ciudadanos gracias presidenta eskerrik asko maneiro jauna

ya hemos debatido efectivamente sobre esta materia efectiva y lamentablemente sobre esta materia

y se hace complicado no repetir algún argumento quizás el primero

es lamentar que no ha sido el empleo no ha sido la economía

a la sociedad vasca aquellos sobre los que el partido en el gobierno el partido que sustenta al gobierno ha puesto el acento como primera iniciativa en esta cámara la primera iniciativa legislativa del partido nacionalista vasco

bildu ha sido la derogación de la conmemoración del estatuto la conmemoración del entendimiento ha sido derogar aquello que nos une

a los vascos ha sido la ruptura de la celebración del acuerdo porque hay que recordar una y mil veces cuántas veces sea necesario que el estatuto de gernika que en el estatuto de gernika se acordaron

entre la inmensa mayoría de la sociedad vasca entre los que eran nacionalistas y los que no lo eran y ustedes el partido nacionalista vasco

sino que han faltado a la palabra dada en un indisimulado homenaje si me lo permiten decir así al señor egibar traeré a colación unas frases

no como nostalgia sino como recordatorio y como justificación de lo que significa faltar a la palabra dada un insigne diputado entonces del partido nacionalista vasco decía si de algo hacemos gala es de cumplir la palabra dada y que nosotros entre otros muchos precedentes tenemos el precedente de ese gobierno vasco en el exilio tan denostado y seguía hablando de los derechos de los pueblos

un nivel autónomo que fuera por lo menos aquel que consiguieron nuestros mayores en el período republicano y tengo que confesar que efectivamente este estatuto ha alcanzado aquel nivel en la mayor parte de los temas fundamentales que trata en algunos incluso los ha superado esto manifestaba en el año mil novecientos setenta y nueve xabier arzalluz y la realidad

es que el estatuto estableció una comunidad política que nunca antes había existido en la historia de euskadi una comunidad política

y lo demás todo lo demás son ensoñaciones todo lo demás son ficciones históricas legítimas pero que no dan cuerpo a la euskadi política porque cabe preguntarse sino

sin contenido histórico sin contenido político cabe preguntarse cómo construimos euskadi en base a un

a una historia trufada de ideología del siglo diecinueve que ustedes una y otra vez

y la realidad que también hay que recordar es que con las revoluciones liberales con la democracia contemporánea nació el ciudadano nació y se le dotó de contenido al concepto de ciudadanía de ciudadano

el individuo como sujeto de derechos y deberes y el viento de la historia con esas revoluciones liberales

de pueblos de clanes o de tribus la realidad es que el estatuto de autonomía del país vasco

en euskadi por primera vez en nuestra historia moderna pero en toda nuestra historia

de ciudadanía se le dotó de contenido político en euskadi y además lo hizo y esto es lo más importante también con un acuerdo

con un consenso jamás alcanzado entre vascos y por eso la derogación de la celebración del consenso entre vascos es un profundo error no solo histórico no solo de presente sino también de futuro

tan machacada por el distanciamiento y por el enfrentamiento

a aceptar por responsabilidad del partido nacionalista vasco junto con bildu se niega a celebrar el consenso y el acuerdo y la realidad insisto más que les pese es que euskadi nace por primera vez en su historia nace como comunidad política

de autonomía y la realidad es que ustedes se niegan a celebrar el nacimiento de euskadi como comunidad política y todo lo que eso conlleva hoy es un día triste para aquellos que creemos en el acuerdo

y en la euskadi de la ciudadanía tendrán que asumir sus responsabilidades el partido nacionalista vasco y bildu no de lo que sucede hoy

para el mañana muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

triste para este parlamento porque con la votación que acaba de realizarse se ha negado a sí mismo su propio origen y de alguna manera también su propia esencia porque este parlamento nace y cobra sentido

en el acuerdo por el que el veinticinco de octubre de mil novecientos setenta y nueve

en referéndum y con una amplísima mayoría constituir a euskadi como comunidad política y recuperábamos así nuestra capacidad de autogobierno y definíamos el marco en el que queríamos convivir personas que pensábamos y sentíamos diferente nada más y nada menos por eso sinceramente creo que no pueden sentirse orgullosos los grupos que han ganado esta votación por lo menos usted el lehendakari y ustedes señoras

del pnv primero por la desautorización que supuso el que presentaran esta proposición de ley para derogar el día de euskadi después de que su gobierno

solo iba a servir para dividirnos poco les importó

lo hicieron impulsados por sus complejos no fuera ser que bildu les adelantara por el arcén soberanista que parece su máxima preocupación

obsceno que con la que está cayendo con lo que está pasando

la primera ley ordinaria que sale aprobada en este parlamento en esta legislatura no sea para atender eso que está pasando para dar respuestas a las consecuencias de la crisis sino para suprimir

cómo se lo van a explicar a los miles de personas que viven

y que seguro que esperaban una cosa bien diferente de todos ustedes porque aquí no se ha legislado para resolver sus problemas

quién es más soberanista gran preocupación ciudadana tercero porque además suprimen la celebración del día del estatuto sin ser capaces de presentar alternativa alguna porque no la tienen porque no la hay si no

de suscitar más consenso ciudadano en euskadi para ser conmemorado cívicamente con naturalidad

el estatuto sigue constituyendo el acuerdo más amplio alcanzado nunca

y no se puede jugar a deslegitimar permanentemente ese amplísimo acuerdo aduciendo su incumplimiento porque no es más que una excusa barata y es que ustedes sobre todo ustedes señores y señoras del pnv igual que hacemos nosotros debieran poner en valor

más que lo que falta por transferir que es bien poco lo mucho que nos ha permitido construir porque gracias al estatuto de gernika tenemos osakidetza y tenemos un sistema educativo vasco

y e i te be y lanbide y hemos construido un país próspero y una sociedad que progresa con unos niveles de

o es que esto nos ha venido de la nada no esto lo hemos podido hacer gracias a la capacidad y a las herramientas que ha puesto en nuestras manos

y además ustedes más que nadie debieran ponerlo en valor porque han gobernado este país durante treinta años o dónde creen que está sino

no viene de ningún mandato divino ni de tradiciones

y no se puede ser tan desagradecido no se puede tener una visión tan corta del recorrido que ha hecho este país y la sociedad vasca porque reducir el estatuto a un listado de transferencias como hacen ustedes para desprestigiarlo

encierra una visión limitada y mercantil de lo que significó y sigue significando el acuerdo estatutario de hace treinta y cuatro años porque es no solo la expresión de los anhelos de generaciones de vascos y de vascas que lucharon por el autogobierno

la plasmación del gran pacto entre vascos y vascas diferentes eso es lo que significa el veinticinco de octubre no una victoria sobre el enemigo no una derrota doliente

y más trascendente la voluntad de una ciudadanía diversa y plural de convivir juntos de iniciar una andadura histórica

y lamento decirlo pero hoy aquí ustedes no han negado solo una fecha no han negado solo una celebración oficial han negado por

el reconocimiento de una apuesta compartida de la sociedad vasca y de éxito colectivo en la que podíamos sentirnos todos cómodos y por eso me preocupa que con la actitud manifestada

siento decirlo se pueda estar negando la posibilidad de un marco de convivencia compartido si no se acomoda al cien por ciento

últimas sería muy mal precedente para ese nuevo y gaseoso estatus político que nos anuncian seguramente queriendo sustituir al estatuto de éxito

orduan zuen akordio politikoak el acuerdo del cambio político y democrático incluía por petición expresa del partido popular la modificación

el veinticinco de octubre ese era el objetivo político y así se hizo y no se habló y ustedes dicen que se respetan las mayorías en una y otra legislatura evidentemente pero es verdad que aquel acuerdo no representaba a la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca y esta es la expresión o qué ha hecho para que aquella mayoría de treinta y nueve baje a veintisiete

no no ha sido eso sino que en este momento tienes o tenemos

de la sociedad vasca a través del voto popular por lo tanto el objetivo de nuestra proposición de ley era derogar una imposición

y volvemos al día en concreto al veintiuno

la víspera de aquella ley que ustedes conjuntamente

aprobaron es el final de una imposición derogamos una imposición

y en este parlamento y se ha hablado en anteriores ocasiones también ha llegado no solamente la hora de cumplir el estatuto después de treinta y cuatro años sino también

las aspiraciones políticas de este pueblo a través de las normas correspondientes no van a mantener eternamente esa estrategia de negociación cumplimiento incumplimiento del estatuto eternamente

se va a actualizar esa voluntad política abordemos el debate beraz

hablamos en poco tiempo sobre el consorcio haurreskolak

es la entidad pública que gestiona las escuelas infantiles cero dos años y esta entidad se constituye gracias a convenios entre el gobierno vasco y los ayuntamientos y el objetivo

sigue siendo ofrecer un servicio educativo e integral dirigido

así como una atención social especialmente para salvaguardar la conciliación de la vida familiar y laboral el consorcio tiene como objetivos

contribuir al desarrollo físico intelectual afectivo social de los niños y

y fija una serie de objetivos concretos promover la colaboración con las familias desarrollo integral ayudando a conocer el entorno

cuáles son los objetivos de este consorcio por qué y para qué se decidió ampliar una oferta

tratar de ofrecer y de responder de manera suficiente a la demanda

se trataba de favorecer una educación preventiva compensatoria de las deficiencias y carencias del niño o la niña que puedan encontrar en su proceso educativo

y que les ayude a un desarrollo evolutivo equilibrado y potenciar una educación global también en la que el objeto de la acción pensamiento del otro el yo afectivo lo racional lo real y lo imaginario sean estén estrechamente indicados en las actividades

creemos que no tenemos que salirnos

de haurreskolak y nosotros estamos convencidos de que el consorcio en estos años ha venido tratando de mejorar de adaptarse a las nuevas realidades y de tratar de prestar un servicio de calidad

proponente nos plantea un debate en relación con la situación de haurreskolak la situación del consorcio

el modelo y que plantea una serie de cambios para según dicen adaptar el consorcio haurreskolak a la nueva realidad a la realidad social actual como si se le pudiese dar

hablando de cambios en los sistemas de matriculación de los plazos de las precuotas de las cuotas incluso de los criterios de apertura cierre una revisión a fondo incluso de todo

que hoy representa y que ofrece haurreskolak nosotros es verdad que hemos estado analizando a raíz de esta propuesta

los cambios en estos años la natalidad va disminuyendo efectivamente

se puede apreciar como en los años dos mil doce y dos mil trece cae la natalidad se estabiliza por debajo de los veinte mil nacimientos anuales estamos hablando de que efectivamente ese

que puedan que nos indiquen por qué puede estar cayendo de alguna manera esa matrícula también efectivamente la crisis hace que haya familias

de su hijo a esa etapa infantil seguramente también es una de las variables pero efectivamente los datos no nos llevan a pensar puesto que se calcula que se estabilice la natalidad alrededor de esos veinte mil nacimientos anuales no nos tiene por qué llevar a pensar

esto tenga que provocar necesariamente una modificación sustancial del modelo referido en este momento del consorcio haurreskolak creemos que el planteamiento tal y como lo trae aquí eh bildu

creemos que no es la manera de abordar en este momento una revisión del consorcio haurreskolak nosotros estamos convencidos de que la dirección del consorcio puesto que es su obligación está permanentemente revisando cuál tiene que ser su

a la realidad de nuestra sociedad y efectivamente seguramente es el momento también de hacer de provocar un debate en relación con los servicios que se están prestando seguramente con las demandas con las nuevas demandas de las familias acomodar de mejor manera la oferta y la demanda tratar de ver exactamente dónde estamos y dónde

hacia dónde queremos ir pero creemos que no se puede cuestionar en conjunto ese modelo que creemos que está perfectamente diseñado y que puede responder a una demanda fundamental

por eso nosotros nos hemos sumado a una enmienda de transacción con el partido nacionalista vasco y con el grupo socialista en el que queremos instar al gobierno a continuar impulsando la oferta educativa en ese primer ciclo de educación infantil atendiendo

insistiendo en que tiene que ser el departamento el consorcio quienes tienen que permanentemente revisar el modelo para adecuarlo de mejor manera

las familias hoy y cuidando que esa adecuación del consorcio haurreskolak responda a las necesidades en este momento de las familias y además

instando al departamento a garantizar los recursos públicos suficientes recursos públicos suficientes efectivamente para avanzar en esas dos líneas calidad

las dos claves que hemos manejado siempre a la hora de hablar del consorcio haurreskolak calidad y equidad en un consorcio en el que los presupuestos de nuestra comunidad dedican alrededor de cuarenta millónes de euros creo los últimos datos se ha ido también

algo más cuarenta y dos millónes de euros seguramente o cuarenta y cinco millónes de euros para los próximos para el dos mil catorce es lo previsto cuarenta y cinco millónes de euros que también necesitamos además de garantizar recursos suficientes que den continuidad a ese consorcio necesitamos también hacer de los servicios públicos servicios públicos sostenibles y hoy efectivamente

las cuotas estamos hablando de que las cuotas solo contribuyen muy pequeña parte a lo que significa el coste global del consorcio haurreskolak nosotros insistimos tiene que ser el departamento de acuerdo con la dirección del consorcio quien arbitre cuál es la mejor manera de adecuar la oferta

requieren de más calidad en el servicio

y además en un momento en el que tampoco las familias pueden asumir cuotas como las que

sí señora ubera yo creo que probablemente esta preocupación que usted muestra de manera reiterada podría

con un diálogo y con un conocimiento mutuo

eso es lo que yo creo que procede porque no veo en el fondo de la cuestión nada de lo que usted está planteando aquí que sea contrario a lo que vamos a mantener la mayoría de la cámara no veo no veo sinceramente yo le voy a traer unas cifras que

a este respecto de haurreskolak no simplemente para conocimiento simplemente para conocimiento mire el presupuesto

millónes de euros pasó de treinta y cuatro millónes a cuarenta y cuatro millónes de euros es decir que a finales de dos mil doce

salía al erario público cuarenta y cuatro millónes de euros el incremento había sido de veintinueve por ciento las educadoras de novecientos once educadoras teníamos mil trescientos seis educadores y educadoras

es una cifra muy muy importante en centros ya se acuerda que cuando empezamos en dos mil trece empezamos con quince centros educativos de dos mil nueve

pasamos de ciento ochenta y siete a doscientos treinta centros educativos o sea un veintitrés por ciento más cuarenta y tres centros nuevos y en plazas

un treinta y dos por ciento más por lo tanto teníamos a finales de dos mil doce

educadores es que interesan estas cifras porque yo creo que estas cifras a usted le pueden hacer ver que realmente tenemos

implementando conforme a las necesidades sociales si no es más que adaptarse a las exigencias sociales

pero tenemos una persona por cada cinco niños lo cual fíjese usted si no estamos hablando de un servicio

niños un educador por cada cinco niños y que además son educadores son maestros y maestras

de lo que sale del coste total el gobierno vasco aporta el setenta y nueve coma treinta y ocho por ciento y las familias el veinte coma sesenta y dos yo comprendo que para una familia que está en paro ciento cincuenta euros de cuota sea una cosa

también y además sobre todo es que no sé a dónde más va a ir el gobierno el gobierno tiene un setenta y nueve coma treinta y ocho no me corresponde a mí defenderlo pero ya quizás sea la costumbre

que realmente el hecho de que haya un setenta y nueve coma treinta y ocho por ciento que aporta el gobierno he de decirle señora ubera que a mí también me preguntaban mucho de esto cuando

y me preguntaba y me decía que tenía que poner más el gobierno el gobierno pone

lo ponen las familias por lo tanto no sé a dónde más a ir

por eso hemos suscrito una proposición

con el grupo popular y con el grupo nacionalista para que efectivamente el gobierno siga

ajustando su oferta a las demandas sociales que es en definitiva un poco lo que usted dice

diseccionada pero en global viene a ser lo mismo es decir el gobierno tiene la obligación de siempre seguir pensando para garantizar

ha habido un descenso de natalidad y es verdad otra cuestión que aquí no se ha tocado pero que es cierta y es que habiendo familias con algún miembro

esas personas optan por quedarse con el niño o la niña en casa una cuestión que efectivamente debiera preocuparnos porque realmente

de cero dos obviamente cuatro meses dos años pueda estar en una haurreskola

supone una ventaja comparativa para él más importante aún si procede

y este es uno de los objetivos precisamente de la europa dos mil veinte es decir trabajar en equidad en dignidad en igualdad de oportunidades y una

para trabajar en esa igualdad de oportunidades es sin duda la educación infantil y esta comunidad tiene muy a gala el hecho de que tiene dos años la edad de dos años escolarizada al cien por ciento cuando es uno de los objetivos fíjense ustedes de la europa dos mil veinte conseguir

nosotros ese objetivo lo tenemos absolutamente superado y el objetivo del cero dos de cuatro meses dos años que es fundamentalmente el grupo de edad que

y otros centros privados que no concertados porque trabajan con subvención

es decir que se puede decir se puede llegar a decir que toda la demanda está siendo satisfecha absolutamente toda la demanda

pequeñito en casa pero es verdad que el gobierno tiene que estar muy alerta como dice también la señora ubera tiene que estar muy alerta

en las que se producen disfunciones porque se producen porque lo cierto es que objetivamente en este momento haurreskola está ofertando más plazas

pero a lo mejor no hay coincidencia en el lugar donde se produce la necesidad y este es un tema que vamos arreglando progresivamente pero que todavía obviamente

en determinados lugares de las capitales de los territorios en algún caso en bilbao se arregló mucho se ha arreglado mucho en vitoria y había mucha más necesidad

remanentes excedentes de plazas en otros lugares y esto es lo que tiene que estar mirando constantemente el gobierno porque tiene todavía ayuntamientos que quieren entrar en haurreskola y otros ayuntamientos que queriendo entrar en haurreskola

han decidido esperar porque tienen que aportar ciertamente lo que significa la infraestructura por eso ese reajuste permanente lo tiene que hacer la administración pública a la vista de todos los datos por eso no observo diferencia

y lo que nosotros décimos no la observo como para hacer un deslinde de esta parte de la cámara está a favor y esta parte de la cámara está en contra

concretamente dónde usted ve la diferencia las educadoras tienen un buen salario

las mismas cosas y yo creo que hay un buen servicio

a que se incorpore al tenor general o que en su caso nos diga concretamente

en qué punto concreto ha de trabajar diferencialmente el gobierno porque en matriculaciones los niños se matriculan cuando está abierta

por lo tanto tasas si hay que bajar pues entonces habrá que ver de dónde

yo creo que un reparto como el que le he dicho ochenta veinte no me parece descabellado nada más yo creo que tenemos que cuidar mucho este servicio

no era nuestro modelo pero el modelo sigue siendo el que se implantó y el modelo que se implantó creo que lo hizo eusko alkartasuna señora ubera

era establecer puertas abiertas en la escuela pública como usted recuerda estableciendo un lugar esencial para

y pensamos que tenemos un servicio que nos da una ventaja comparativa y competitiva al país vasco y que debemos todos

la oferta de plaza del consorcio haurreskolak es de casi unos ocho mil como ya se ha comentado cuando solo se ocupan poco más de la mitad

beraz plazen arazo hori ez da erreala ubera andrea los recursos públicos están garantizados para seguir avanzando en la calidad y la equidad de nuestro sistema educativo

adecuándose a las necesidades de las familias adibide bezala

upyd votará a favor de la transaccional que han firmado la mayoría de grupos gracias eskerrik asko maneiro jauna

insta al gobierno vasco a continuar impulsando la oferta educativa del primer ciclo de educación infantil guztia aquí no se habla de haurreskolak partzuergoa

zeren gero hitz egiten da teniendo en cuenta la demanda real existente en la actualidad y cuidando especialmente la adecuación de las haurreskolak a las necesidades de las familias

que seguramente podrá traer otra vez el debate y con algo más concreto pero que ha hecho una interpretación

de lo que es la propuesta de transacción tremendamente imaginativa porque haurreskolak es oferta fundamentalmente cero dos

y por lo tanto eso es lo que dice la enmienda impulsar la de educación infantil recalando especialmente

hace muy poquitos días tuvimos un debate acerca de las subvenciones a la privada oferta privada y de las haurreskolak en la comparativa y usted pudo ver cómo fue censurado el gobierno anterior el gobierno

fue censurado por incrementar un veintinueve por ciento haurreskolak

en las subvenciones a la privada por tanto si este gobierno no va a hacer no va a continuar la política de impulsar

habremos de reclamárselo por que la primera obligación de una administración pública es con la educación pública porque es la única forma que tiene de garantizar

y eso solo lo puede hacer la administración pública la privada puede estar o no estar marcharse mañana y nadie ha de reclamárselo a lo público sí pero le voy a decir una tarea que tiene pendiente las haurreskolak y que no es tan tangible pero

la tarea que tiene pendiente y en la que tenemos que trabajar es en la vinculación clarísima del proyecto educativo de las haurreskolak con la educación pública ahí tenemos que estar y ahí todavía estamos

hay que vincular las haurreskolak con los centros públicos y así establecer una red completa no solamente lo que significa oferta en matricula

forma de continuar etcétera por tanto tenemos campo para trabajar así que esperemos poder seguir debatiendo de estos y otros temas nada más y muchas gracias